aunque resulte incómoda o antipática verdad y transparencia porque ya hemos sufrido demasiado tiempo la opacidad el ocultismo y el camuflaje de la realidad creíamos que esta comparecencia tenía pleno sentido no solo porque desde eh bildu hayamos manifestado de forma reiterada nuestras dudas e incluso nuestra oposición al proyecto del tren de alta velocidad

sino porque haciéndonos eco por ejemplo del último informe del gabinete prospección sociológicas en las que se analiza

nos encontramos con que un sesenta y siete por ciento de la población encuestada manifiesta conocer poco o nada del proyecto del tren de alta velocidad nos parece un dato relevante de alguna manera incidiría en aquello que el lehendakari señalaba como importante dar a conocer explicar a la ciudadanía qué es el tav qué nos está costando el tav cuándo va a estar

vamos a construir el tav cómo se está construyendo el tav todas esas interrogantes son las que hoy queremos que se puedan responder al menos parcialmente hoy aquí

esta voluntad de conocer más de que la ciudadanía conozca más sobre lo que significa el conjunto del proyecto del tren de alta velocidad vamos a realizarle en este caso señora consejera

con el tiempo cuándo está prevista en función de la información de que dispone como responsable del gobierno de esta comunidad autónoma la finalización y puesta en funcionamiento

creemos que la pregunta es pertinente porque conocidas las informaciones diferentes que aparecen sobre la ralentización en la ejecución de las obras necesarias tanto en el eje francés el eje dax baiona como en el eje

nos parece que esa demora en los tiempo puede alejar todavía más de lo que ya ha sido la ejecución del proyecto

por tanto cuándo está previsto conectar la y vasca con el trazado español y francés de vía ancha es cierta la voluntad de ejecutar

en caso afirmativo porque así nos ha parecido leer en varios ocasiones en la prensa nos gustaría

que habremos de sumar a las cantidades consignadas en futuros presupuestos de la comunidad autónoma vasca hasta la fecha se consignaban lo relativo a las encomiendas de gestión en el ramal guipuzcoano del tren de alta velocidad si el gobierno vasco quiere ejecutar también las del ramal vizcaíno es evidente que se incrementará la cuantía en el presupuesto

sobre lo que afectará al volumen de los presupuestos cómo piensa resolver su gobierno el acceso a las capitales de la comunidad autónoma vasca habida cuenta de las variaciones surgidas desde su planteamiento inicial supongo que tampoco es falso lo que ha aparecido en prensa sobre las posibilidades de readaptar

de dicho tren habida cuenta de que las estimaciones receptación de beneficios o de dinero

venían en buena medida por la liberalización del suela que provocaba las playas de vías y las posibles edificaciones o construcciones que en ellas se pudiera realizar en lugares que se entendían céntricos en las capitales y que por tanto podrían tener un valor de suelo importante esa era la lógica y esa era una lógica que

de cuál fuera la competencia pudiera con eso paliar o contribuir a hacer más sostenible en términos económicos esta operación si el precio del suelo ha variado si la burbuja económica se ha desinflado en qué medida afecta eso a esta realidad

de una depreciación del valor del suelo y por tanto de una

hay otra serie de preguntas que están relacionadas con el cuánto con los dineros como esta última qué coste maneja su gobierno como coste real total de la infraestructura a su finalización

en mil novecientos noventa y ocho se hablaba de tres mil millónes de euros en el dos mil seis de cuatro mil ciento setenta y ocho millónes de euros

en el dos mil trece cuando solo estaba licitado el cuarenta y dos por ciento de la obra total

se nos habla de un desvío de un sobrecoste de cuatrocientos treinta y siete millónes de euros todo eso solo en lo relativo a la infraestructura sin tener en cuenta la super estructura es decir aquello que tiene que ver con la catenaria las estaciones los apartaderos los sistemas de seguridad los trenes y la entrada a las capitales

o nos iremos encontrando sucesivamente con modificaciones a las que culparemos o de las que culparemos a los imponderables del destino a la casuística

cuál es la cuantía ya tasada en sobre costes en los tramos ejecutados para saber si es cierta esa cuantía que yo he señalado o es mayor o es inferior

sigue manteniendo la señora consejera que obedecen a que fueron fruto de un ejercicio

en cualquier caso ya anticipo bastante peligroso que así fuera qué previsión maneja su gobierno de costes o gastos de mantenimiento del trazado de alta velocidad porque

lo que nadie nos ha dicho es la estimación que tiene este gobierno de su mantenimiento y el mantenimiento puede ser muy elevado y si el mantenimiento en muy elevado repercutirá en alguna manera tanto en los presupuestos aquí no habrá

la responsabilidad y tendrá que ver también probablemente en los precios

como para la mercancía en cuánto puede afectar a las continuas disputas sobre la liquidación del cupo

hay diferencias en torno a la estimación del cupo el gobierno vasco nos hablo de ochocientos cincuenta y uno millónes el gobierno del estado español habla de mil quinientos veinticuatro es decir siempre hay una orquilla de diferencia que hace imposible el acuerdo

cuánto puede incrementar esa orquilla de diferencia o de desencuentro hacer la encomienda de gestión del ramal

y respecto al pago al precio me referiré a una cuestión que no la ha dicho eh bildu que lo ha dicho el portavoz parlamentario del partido nacionalista vasco en diciembre de dos mil trece en el congreso de los diputados el señor aitor esteban

pero insisto en que no repita una y otra vez que el gobierno español está pagando

porque igual se lleva una sorpresa y resulta que por el momento hay unas cantidades muy importantes que sigue adelantando el gobierno vasco y que no se están pasando nosotros estamos

esperamos cobrarlo pero no lo cobramos conclusión lo estamos pagando

está este gobierno en disposición de afirmar que en las obras del tren de alta velocidad que se realizan en nuestro suelo se cumple la ley de prevención de riesgos laborales cree este gobierno que la aceleración

puede incidir en una mayor siniestralidad laboral con resultados trágicos

financiada con dinero público cabe recordar lo hacen bajo el paraguas de los convenios provinciales o sectoriales de la construcción en lo que tiene que ver con el salario y la jornada

por qué se empiezan a utilizar vertederos con el material sobrante sin autorización previa como es preceptivo contemplan los proyectos en curso y los pendientes de iniciar la depuración de las aguas de excavación

dónde se están dirigiendo en la actualidad se está sancionando de algún modo a esas empresas que puedan estar vertiendo aguas derivadas

yendo a los vertederos definitivos o estamos pagando entre todos su contaminación

batasunarentzat den bezala la vertebración interna y la conexión exterior

por una parte se resuelve el problema de conectar por vía ferroviaria de altas prestaciones las tres capitales de la comunidad autónoma

la conexión con iruña estableciendo una oferta de servicios de transporte competitiva especialmente en tiempo de viaje con el automóvil y también con la posibilidad de trasladar mercancías al mismo tiempo se configura esta red como la de conexión con la red europea de ancho internacional

el carácter estratégico de esta nueva red ferroviaria lo ha confirmado la unión europea en todas las reuniones de proyectos que conforman la red prioritaria de rtt

y su inclusión como un proyecto objeto de financiación europea para su desarrollo el marco financiero plurianual contemplado en el mecanismo conector europa reserva para el período catorce veinte diez mil millónes de euros del fondo de cohesión para infraestructuras de transporte de carácter prioritario como es el caso de la y el planteamiento del esquema de redes transeuropeas que por primera vez vio la luz en essen en el año mil novecientos noventa y cuatro y que ha sido confirmado reiteradamente por la comisión europea

interconexiones de las redes de los estados interoperabilidad y acceso a redes para que las personas bienes y empresas puedan beneficiarse plenamente de una comunidad sin fronteras internas

por lo cual todos los modos de transporte pueden considerarse en su contribución a una red integrada por tanto el gran sentido que tiene esta infraestructura que nos conecta con europa una infraestructura del siglo veintiuno que pone en valor nuestra condición europea y que nos va a permitir optimizar mejor la red existente y en consecuencia impulsar un nuevo modelo de movilidad una movilidad mucho más sostenible la actual red ferroviaria fue construida entre el

fue diseñada con criterios de economía en su infraestructura con parámetros de aquella época pero insuficientes para poder hoy competir y ser alternativa

las viarias a las limitadas características de los trazados existentes que por ejemplo nos hacen que para ir de bilbao a donostia en tren se necesiten casi tres horas de tiempo

diferentes por una parte como usted sabe bien también tenemos la red

y estos dos anchos de vía además de ser incompatibles entre sí

es decir que tenemos una frontera ferroviaria cuando todas las demás fronteras se están superando tenemos una frontera ferroviaria que penaliza enormemente la oferta de servicios ferroviarios que nos conectan con iparralde y con el resto de europa las instituciones vascas conscientes de esta situación iniciaron en

una serie de estudios de alternativas conceptuales de trazado para modernizar la red ferroviaria entonces existente para todos esos esquemas alternativos que se analizaron

se procedió a la evaluación socio económica de cada una de las alternativas se realizó la evaluación de los impactos medioambientales

la evaluación de alternativas se realizó utilizando el entonces denominado modelo regional del país vasco construido en mil novecientos ochenta y seis

este modelo tenía por objeto simular y evaluar la economía espacial del país y servía como herramienta de análisis para anticipar los efectos de las políticas territoriales y de transporte tras todo este proceso se eligió una alternativa que se constituyó para el entonces departamento de política territorial y transportes

estudio sistemático y por aproximación sucesiva de los trabajos de definición de una infraestructura compleja tanto por su intrínseco contenido de ingeniería ferroviaria como por características orográficas y medioambientales de nuestro territorio este proceso que aquí he tratado de resumir sirve además para que a primeros de mil novecientos noventa la administración vasca presente

un proyecto de nueva red ferroviaria que se constituyó ya en mil novecientos noventa y cuatro en un eslabón clave del corredor atlántico de red prioritaria transeuropeo

un largo proceso de implicación y de intervención directa de la administración vasca

como red transeuropea prioritaria de interés general para la administración del estado se llevan a cabo una gran cantidad de trámites

de información pública de audiencia a administraciones que no les voy a aburrir en relatar con detalla pero que si quiere le puedo dar en definitiva

quedó configurado por un esquema global de ordenación orientado a resolver las necesidades de la demanda de transporte desde tres niveles que se potencian y complementan entre sí a través del sistema

una nueva red de carácter transeuropeo que conecta la comunidad autónoma con el resto de europa cohesionando el territorio de la comunidad autónoma formando parte

y resolviendo además los accesos a los puertos de bilbao y pasaia

y una red ferrocarril metropolitano y de sistema tranviario para las relaciones internas de las áreas metropolitanas al ser una infraestructura entro en las obras señor matute ya veo que se lo sabe y se aburre

al ser una infraestructura de interés general corresponde a la administración del estado la financiación y ejecución de las obras creo que esto es importante recalcar

insisto al ser una infraestructura de interés general corresponde a la administración del estado la financiación y ejecución de las obras el gobierno vasco

para el transporte de personas y bienes se ha implicado en la construcción de esta nueva red ferroviaria

se implique no solo en la fase de planificación y proyecto sino también en la construcción de la infraestructura de la red transeuropea como lo está haciendo este gobierno y los anteriores

compete y obliga en último término a la administración general del estado el gobierno vasco ha considerado necesario coadyuvar al cumplimiento del compromiso de esta red transeuropea que por cierto

como estableció europa y ese compromiso por parte del gobierno vasco se traduce en la implicación directa en la ejecución

en base a esta implicación el veinticuatro de abril de dos mil seis

entre la administración general del estado la administración general de la comunidad autónoma del país vasco y el administrador de infraestructuras ferroviarias adif para la construcción de la nueva red ferroviaria en el país vasco recuerda usted cómo era el gobierno el veinticuatro de abril de dos mil seis verdad señor matute yo también

desde bergara hasta irun así como el tramo de inserción con la ciudad de donostia asimismo el gobierno vasco asumió la dirección facultativa de las citadas obras

necesarios en orden a la obtención de los terrenos precisos para el establecimiento de la nueva red ferroviaria y sufraga la oficina de gestión del proyecto expropiatorio

en el convenio el coste inicialmente previsto de estas obras era de mil seiscientos cuarenta y dos millónes de euros es decir

por supuesto de buena fe faltaría más pero es una estimación inicial qué quiere decir eso quiere decir que todavía no hay proyectos constructivos redactados por tanto es una estimación inicial que no es un proyecto de ejecución material es una estimación inicial todavía ni siquiera se habían realizado los correspondientes sondeos del terreno ni por tanto los proyectos constructivos de la infraestructura los proyectos constructivos se redactaron entre los años dos mil ocho y dos mil once y el presupuesto de licitación de los diecisiete tramos de plataforma entre bergara y astigarraga

no obstante le señalo resumidamente la justificación de actualización de cifras destinadas a esta inversión en primer lugar y como también tuve ocasión de explicarle en otra comparecencia

el convenio de dos mil seis hablaba de estimación inicial sin todavía existencia de proyectos constructivos como digo reiteradamente a ello hay que añadir el coeficiente anual de actualización de precios legal cada año hay que hacer una actualización de precios como usted bien sabe además el iva ha cambiado hemos pasado de un iva del dieciséis por ciento al veintiuno por ciento

la mayor exigencia de integración paisajística y medioambiental planteada por este gobierno respecto de la declaración de impacto ambiental en el año dos mil condicionantes geotécnicos y modificaciones de estudio informativo por cambios de trazado en algunos tramos y sustitución de terraplenes por viaductos

para terminar en esta primera intervención le diré

mixto permitiendo así la eliminación de la existente frontera

y la consiguiente ruptura de carga la línea está diseñada para permitir velocidades máximas en el intervalo doscientos treinta doscientos cincuenta kilómetros hora para los trenes más rápidos y con velocidades en el intervalo de noventa ciento diez para los trenes de mercancías

que en conjunto totalizan uno coma seis millónes de habitantes localizándose las estaciones en ámbitos de alta accesibilidad metropolitana y de cercanías

un fácil acceso de los habitantes del área funcional citada además de posibilitar la conexión hacia iruña por insistir en el tema de las mercancías creo que es un punto muy importante e interesante estamos viendo en centro europa cómo están evolucionando las autopistas ferroviarias veíamos recientemente como la autopista ferroviaria desde luxemburgo hasta montpellier

y vemos como la administración francesa ha concesionado la explotación de la autopista ferroviaria entre

nuestra intención y en eso estamos trabajando es que esta autopista ferroviaria desde lille pueda continuar hasta gasteiz y esto solamente será posible con la y en funcionamiento me hacía usted algunas preguntas sobre cuestiones que creo

algunas preguntas es una manera como otra cualquiera que eran diecinueve preguntas bastantes concretas de la cuales no he obtenido respuesta en ninguna de ellas agradezco

pues le pregunta a usted me parece que la lógica es bastante aplastante y desde luego es bastante

yo no le voy a volver a preguntar las diecinueve preguntas porque como esto se graba ya está en el diario de sesiones

que yo he venido a aquí a hacer un debate global porque creo que la cuestión es global y que tiene muchas aristas yo lamento profundamente

sí le adelanto que como el saber no ocupa lugar y en mi cabeza todavía hay espacio para mucho más conocimiento sobre este tema y otros muchos volveré con esta historia tantas veces como haga falta y si no es el lehendakari quien me conteste será usted porque es su obligación no lo tome como

tómelo como una obligación para con los ciudadanos que como le he dicho y nos son datos nuestros son datos del propio gobierno vasco

desconoce lo que va a afectar el tren de alta velocidad desconoce cómo se está gestando desconoce cuánto va a costar desconoce cuándo se va a poner en marcha

usted sabrá y si no se lo pueden aclarar sus compañeros o el partido que

de ocasiones en las que este parlamentario se ha posicionado en contra del tren de alta velocidad incluso estando en el gobierno incluso por escrito en el acuerdo de gobierno que se firmó aparecía una salvaguarda que tenía que ver con la posición discrepante en torno al tren de alta velocidad si era una manera de evidenciar alguna incoherencia espero que esta aclaración le sirva para intentar buscar

renta bastante poco me hablaba no dándome respuestas y haciéndome una historiografía bastante interesante que yo le agradezco y que además estaré

los tiempos de los trazados y sobre la antigüedad de los mismos me hablaba también

no creo que sea difícil convenir en esto al menos quizás en todo lo demás sí

puesto en vigor en el año noventa y tres barra noventa y cuatro en cuanto a lo que tiene que ver de avance

puede haber quedado un poco desfasado cuando lo que vemos es una población bastante más empobrecida de lo que pensaba estarlo

y una realidad industrial que cada vez y por desgracia se asemeja más a un páramo industrial que a una

esa es la realidad a día de hoy por eso nosotros le hacíamos preguntas muy claras y le hacíamos una pregunta que era muy clara

si este proyecto estaba pensado hace veinte años y la realidad ha cambiado

no se cree este gobierno que pueda ser oportuno replantearse esos esquemas porque ese tráfico mixto de mercancías y personas es un tráfico que como bien señala

por ser capaz de mover a personas y de mover a mercancías de mover a personas en una especie de metro de cercanías y de alta velocidad porque la conexión burgos vitoria usted sabrá igual que yo que no va a ponerse en funcionamiento al menos eso ha dicho el gobierno al que tengo que preguntar al gobierno de españa y con el que usted tiene más hilo directo que yo sea dicho de paso

la obra vasca y usted no me ha dicho cuándo va a estar terminada supongo que para curarse en salud supongo que para no pillarse los dedos tampoco me ha dicho el coste total me ha hablado de unas estimaciones iniciales

de la desviación actual no me ha hablado de que con el cuarenta y dos por ciento de la obra como le he señalado ya hay unas desviaciones importantes y las achaca

es curioso la actualización de los precios en esto funciona en los salarios ya no tanto eso ya si acaso se deprecian o se demedian pero no importa porque a mí me parece que en este proyecto y yo voy a intentar seguir con las preguntas para no hacer un debate que en todo caso tendría más sentido en la parte final a mí me parece que este proyecto para muchas de las personas que lo han pergeñado que lo han ideado

porque merece la pena en sí mismo el problema es que le merece la pena a los que están obteniendo unos beneficios brutales de construir el tren de alta velocidad y probablemente nos merezca muy poco la pena a los que lo estamos pagando porque no sabemos cuál va a ser la tarificación

que en todo el trazado de alta velocidad del estado español las mercancías no tienen sitio no tienen espacio y esa es la realidad no me la estoy inventando yo si usted analiza progresión en el transporte de mercancías en los trenes de alta velocidad verá que en el estado español que es el segundo país del mundo con más kilómetros de alta velocidad no existe no pesa no tiene dimensión

a través de la inyección directa de dinero de las arcas públicas nuevamente para abaratar los precios de los billetes y así incentivar que se utilice el tren de alta velocidad eso está pasando en el trazado de madrid valencia y está pasando en otra serie de trazados y a eso es a lo que le preguntaba que me diera respuesta porque supongo que la política también es prever usted me hablaba cuando me hablaba de las estimaciones que se habían hecho con buena fe

pero es que eso enlaza directamente con otra realidad pues como se ha hecho con buena fe dios proveerá que dice un amigo mío cristiano ya si acaso dios proveerá

ya veremos cómo se hace ya veremos cuándo se termina ya veremos qué está pasando en los

ya veremos si cobramos vía cupo o no lo que de momento estamos adelantando ya veremos dios proveerá esa es la respuesta de este gobierno yo no voy a entrar con el rollo de la confesionalidad ni nada por el estilo pero hombre me entenderá que es una respuesta al menos poco rigurosa y científica que habrá otras y que igual me las puede dar y yo se las agradeceré pero a día de hoy su definición

a las diecinueve preguntas que le he planteado ha sido que me tenga que agarrar a esto a la buena fe

sus políticas y que pagan también con sus impuestos nuestra acción política

le voy a reiterar únicamente tres cuestiones por si tengo esta vez más suerte al plantearlas de modo general quizás la tenga a la hora de definir este proyecto como viable como necesario como útil se habla de tres

la rentabilidad económica la rentabilidad social y la rentabilidad medioambiental no cree en términos de rentabilidad económica

se van a producir que no nos sabe decir el coste total del proyecto que no nos sabe decir qué políticas va haber que realizar para incentivar el uso de dicho transporte

la mayoría de la población una parte muy importante lo está pasando realmente mal para llegar a fin de mes no digo ya para llegar a vitoria gasteiz en media hora sino para llegar a fin de mes en cada uno de los meses de su vida

tranquila sobre cómo estamos destinando ese dinero para que este viaje a ítaca

empresas relacionadas con alguna trama poco decorosa como la de los sobres o empresas

me habla de la rentabilidad social o hablamos de la rentabilidad social insisto no cree que con una industria que desde luego ha cambiado mucho desde hace veinte años y no para bien una población que se ha empobrecido bastante probablemente más de lo que deseáramos todos y todas desde cualquier posición política no cree que hay que plantearse quién va a poder hacer uso de dicho tren no cree

no le parece difícil que si no somos capaces de hacer una estimación de cuánto va a costar el mantenimiento yo le puedo dar una asturias tiene un proyecto de trazado parecido al nuestro con un setenta por ciento del trazado en terrenos no llanos en terrenos que ni siquiera transcurren en superficie es decir por viaductos y túneles

según sea la fuente que se tome podríamos calcular que estamos hablando de catorce millónes de euros anuales en mantenimiento

otros modos de comunicación como si no existiéramos o no estuviéramos conectados con españa por tierra mar y aire y con el mundo a través de otras redes

beneficiosa o al menos compatible con nuestra apuesta por la sostenibilidad ambiental realmente lo sigue pensando

yo creo que es el momento de que este pozo sin fondo que se ha convertido la alta velocidad deje de suponer una rémora para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas y probablemente lo mejor que podamos hacer es que esto deje hacer tantas aguas como el túnel de pajares

muchas gracias presidenta buenos días a todas y a todos buenos días

lehendakari hemos debatido en numerosas ocasiones sobre la cuestión y desde upyd por lo tanto repetiremos básicamente los mismos argumentos que hemos

en primer lugar y puesto que eh bildu pide al gobierno vasco paralizar este proyecto y utilizar ese dinero para satisfacer las necesidades reales de la sociedad vasca

íntegramente el estado obviamente esto no quiere decir que al menos en nuestro caso pensemos que no haya que analizar permanentemente

qué se ha hecho qué se está haciendo y qué puede o debe hacerse en el futuro por el simple hecho de que no la pagamos los ciudadanos vascos o que la paga

y recordar que ese dinero no podríamos dedicarlo a otras cuestiones como permanentemente plantea eh bildu en sus distintas iniciativas

y resumir la posición de upyd sobre la cuestión no estamos ni con los que proponen paralizar y abandonar definitivamente las obras del tav en euskadi porque tal cosa es un disparate ni con los que durante largos años han derrochado dinero público

en esta infraestructura en muchos casos por razones exclusivamente electoralistas o clientelares estamos

en euskadi para conectarnos mejor a europa y al resto de españa pero que no están dispuestos a abandonar lo prioritario y lo prioritario a día de hoy en el conjunto del país es destinar

el estado de bienestar las políticas sociales y la salida de la crisis económica eso es lo prioritario a día de hoy en euskadi y en el conjunto de españa la infraestructura del tav en euskadi si bien hoy en día

dado que las obras ya están ejecutándose aunque no solo por eso consideramos una necedad paralizarlas proponer paralizarlas

olvidarlas o intentar negar la realidad de los hechos entendemos que esta infraestructura es necesaria para una buena comunicación con el resto de españa y europa pero también entendemos que no podemos olvidar que actualmente el ritmo de construcción no corre tanta prisa porque aparte de la situación de dificultades presupuestarias

o al menos no hay noticias que justifiquen proponer al gobierno acelerar las obras ni al gobierno vasco ni al gobierno de españa aunque sí cabría

se prioricen los tramos establecidos por la unión europea que fue algo que ya votamos en esta misma cámara hace apenas unos meses cuando se votó

a impulsar las actuaciones que aseguren el cumplimiento de los criterios y prioridades establecidos por la unión europea en materia de infraestructuras ferroviarias de alta velocidad

de la red de alta velocidad el desarrollo de la red de alta velocidad en españa en ningún caso ha respondido a un ejercicio ordenado de jerarquización priorización sistemática y sistémica basada en criterios objetivos esta es una afirmación que recogía la última iniciativa del grupo socialista que debatimos sobre la cuestión y nosotros estamos plenamente de acuerdo se puede decir que en ningún caso ha respondido a un ejercicio ordenado de jerarquización

o se puede decir en palabras más entendibles que ha sido en demasiadas ocasiones

una chapuza monumental en nuestra opinión en españa se han impulsado líneas de ave no justificadas en absoluto por razones en demasiadas ocasiones

en españa se han impulsado líneas de ave allí donde no debían haberse llevado a cabo

índole interesaba políticamente a algunos llevar el ave a un determinado lugar contra todo criterio medianamente serio y riguroso en españa se ha producido verdaderas cacicadas en esta en españa se han tomado determinadas decisiones en relación a este asunto sin otro propósito que beneficiar a determinados partidos políticos a determinados poderes regionales a determinada comunidad autónoma a determinada provincia a determinada ciudad incluso a determinado pueblo o a determinado alcalde por simples

indaga o simplemente observa a donde han llegado y por qué determinadas líneas solo puede llamarse corrupción y dispendio injustificado de dinero

o un desarrollo evidentemente asimétrico y desequilibrado de la red sino que realmente se ha producido un desarrollo de la red a todas luces excesivo y en caso concretos absolutamente disparatado de hecho

de dinero público en este asunto es decir se ha detraído dinero público de la educación de la sanidad de las políticas sociales

y de todo ello evidentemente son responsables el partido popular y el partido socialista obrero español llegados a este punto evidentemente no se trata de pedirles a los populares y a los socialistas que pidan perdón por sus excesos pero si al menos que llegados al punto en el que nos encontramos no vayan a cometer de ahora en adelante nuevos errores o despropósitos en general se trata de que todos aprendamos de lo sucedido y sin renunciar cada cual a sus principios fundamentales sí al menos sepamos reconocer que demasiadas cosas se han hecho

en nuestra opinión el gobierno de españa debería llevar a cabo una revisión a fondo de las inversiones del estado en materia de alta velocidad y debería

a estudios vinculantes de rentabilidad de necesidad de demanda social y de conveniencia también económica cosa que en el pasado no se ha hecho en demasiadas ocasiones no se ha hecho en absoluto no olvidemos que estas inversiones las financian todos los ciudadanos con sus impuestos pero no todos los ciudadanos ni todas las familiar se pueden permitir coger cosa que no suele decirse ni recordarse y esto obviamente debe tenerse en cuenta analizando en cada caso si la inversión planteada es realmente necesaria

muchas de estas inversiones no han cubierto las necesidades reales de la gente han creado deuda

han creado problemas nuevos algunas obras y algunos tramos se han impulsado únicamente para favorecer determinados intereses particulares tampoco podemos olvidar que las inversiones en alta velocidad suele hacerse a costa de las inversiones en la red convencional

se hacen evidentemente a costa del impulso de otras políticas públicas que nosotros consideramos más prioritarias y más urgentes nosotros no queremos que se abandonen todas las inversiones aprobadas

para que no repitamos los errores del pasado puesto que no podemos corregir determinados dislates cometidos y determinadas actuaciones injustificadas

del pasado respecto a las obras en euskadi nosotros no creemos que la y vasca vaya a quedar aislada

de presentar los retrasos que puedan darse o se estén dando como

lo dramático es lo que he señalado arriba lo dramático es la mala priorización la mala planificación

las obras innecesarias llevadas acabo el dispendio de dinero público las razones no confesadas ni confesables para acometer determinados tramos o acometerlos antes que otros esto es realmente lo

determinados retrasos en un contexto de crisis y recursos escasos son asumibles la corrupción y el derroche de dinero público nunca los recursos públicos son escasos y por lo tanto se trata de dedicar esos recursos a realmente lo importante no podemos olvidar por otro lado

de alta velocidad en euskadi entre veinte y treinta y cinco millónes de euros nada más y nada menos en conclusión dadas las limitaciones presupuestarias es mejor plantear o asumir y no es ningún drama ciertos retrasos en la construcción

que no en políticas sociales impulso a la actividad económica o promoción del empleo de hecho dada la situación económica en la que nos encontramos lo extraño sería que la construcción del ave o del tav no sufriera retraso

sí que sería ciertamente extraño en conclusión y termino nosotros qué es lo que décimos al gobierno de españa y también al gobierno vasco les décimos lo siguiente prioricen los tramos realmente importantes los tramos vascos son más importantes que otros muchos sin duda pero determinadas políticas públicas son más importantes también que esta infraestructura actúen con transparencia y rigor no

inconfesables den explicaciones en el congreso de los diputados y en el parlamento vasco sobre la cuestión mantengan informada a la ciudadanía sean rigurosos en el uso del dinero público actúen con visión de estado

presidenta con las obras del tav en euskadi por ser una infraestructura

sin pausa pero sin prisa y en todo caso sin olvidar qué es lo realmente importante

el mantenimiento del estado del bienestar el mantenimiento de las políticas sociales atender a los ciudadanos que peor están pasando y luchar contra la crisis económica
eso es realmente lo importante lo prioritario eskerrik asko maneiro jauna tanto en euskadi

lehendakari señora consejera buenos días señorías ustedes los peticionarios de esta comparecencia

y créame no es una buena táctica pedir la comparecencia del lehendakari para podríamos decir pedirle cuentas sobre el derroche

para decirles que ustedes no quieren esa infraestructura primero porque esa opinión ya la conocíamos

y segundo porque es no aceptar la realidad esto sí que es un choque de trenes entre la modernidad y el progreso entre ustedes

sirve para que ustedes se retraten una vez más y para que algún grupo

la equidistancia y se lo dije el pasado mes de diciembre al señor matute la mayoría de la sociedad vasca

representan a quienes representan y tienen esa fijación no quieren la modernidad no quieren la conexión con el resto de españa ni con europa bueno lo que ustedes

la mayoría de esta sociedad lo considera la inversión más importante que va a tener euskadi

en versión del siglo veintiuno y ustedes ya se lo dije querrían que euskadi fuese una isla

créame su fijación llega a unos niveles tan preocupantes que

parlamento me encontré con que usted había formulado una pregunta sobre la publicación

un proyecto de país una conexión internacional le preocupaba que se hubiera publicado ese libro con respecto y con el tema

nos dice por cierto publicación financiada por las empresas que financiaron las jornadas porque el gobierno vasco solo corrió con los gastos de distribución que supongo que los conoce

pero es que hoy además de haber cuestionado esa publicación hoy usted viene aquí a decir que solo el setenta y no sé qué

bastante sorprendente y bastante incoherente con aquella preocupación que tenía usted por la divulgación de un proyecto estratégico como este pero bueno

un poco más hasta dentro de esa coalición

que ha estado a favor de la alta velocidad lo que pasa es que cómo lo diría yo

algo fagocitado y más allá de lo enunciado en la solicitud de la comparecencia expresada en los términos qué va a hacer el lehendakari

ya contestado por la señora consejera entrar en materia

y que se ha considerado un proyecto estratégico en términos económicos

y en términos políticos dicho por el señor esteban en el congreso

como un proyecto prioritario y el presidente de gobierno puede hablar así

porque las inversiones ejecutadas por el gobierno de españa en los años dos mil doce y dos mil trece en un contexto de restricción presupuestaria

y esto representa cerca del cincuenta por ciento del total invertido desde que se iniciaron las obras de hecho señorías la inversión media en dos mil doce y dos mil trece

la del período dos mil seis dos mil once es decir la inversión media de nuestros antecesores el partido socialista reitero el dato

mil millónes de euros inversión en dos años del gobierno del partido popular

pero si quieren como nosotros consideramos que no es

de euros más los trescientos cuarenta y siete millónes de euros ejecutados por el gobierno vasco

o sea seiscientos cincuenta y cinco en el dos mil doce en el dos mil trece ciento noventa para la y vasca y trescientos cincuenta que el gobierno vasco ha ejecutado al ramal

la previsión es ciento noventa millónes cifra similar al de dos mil trece y además trescientos setenta y siete millónes para los tramos de valladolid venta de baños burgos vitoria

pero también es verdad que los pagará el estado a través de mecanismos

pero es interesante reiterarlo se financia con los presupuestos generales del estado porque al final sale de los impuestos de los españoles que financian todas las partes de la y vasca es decir

se paga así también el tramo guipuzcoano los vascos contratan

adjudican y firman las certificaciones que finalmente va a pagar el estado por cierto cuando se dice que hay recursos europeos

hay que precisar que de los cuatro mil y pico millónes que cuesta la y vasca hasta ahora señorías europa

estas son las cifras que suponen un enorme esfuerzo en un momento de gran dificultad presupuestaria decirles también

que llevaba sin convocar desde dos mil seis han oído ustedes bien dos mil seis se reunió el pasado doce de diciembre y se ha vuelto a reunir en enero el día dieciséis

para tratar los accesos a las capitales porque también se han puesto en marcha las comisiones para el acceso a las ciudades

a bilbao y el proyecto de entrada a vitoria está ya en exposición pública

presupuestario de coordinación entre los dos gobiernos también hemos tenido que oír que se ha tardado demasiado cosas veredes

esta comparecencia me da la oportunidad de más allá de las lógicas discrepancias que hay en cualquier proyecto compartido en este caso por los gobiernos que como lo ha dicho la señora consejera es un hecho sin precedente

me da la oportunidad de decir que este proyecto une al gobierno de españa con el gobierno vasco

vertebra españa y vertebra europa claro que a ustedes señores de bildu no les gusta lo comprendo por eso no les gusta porque

y porque une muchas gracias eskerrik asko iturmendi andrea

de tratar en esta cámara el proyecto de tren de alta velocidad los socialistas no rehuimos debatir sobre la y vasca personalmente para mí como portavoz de infraestructuras del grupo parlamentario socialista es un placer

un proyecto que nos va a situar en el mapa de la modernidad del transporte por ferrocarril que interconectará nuestras capitales nos conectará con el resto de españa y europa

estas fueron mis primeras palabras hace un año en esta tribuna en mi primer debate parlamentario y hoy sigo manteniéndolas

y hoy nos encontramos un año después ante una solicitud de comparecencia del lehendakari por parte de

para detener el despilfarro económico en el proyecto del tren de alta velocidad como diría mi abuelo el mismo perro pero con distinto collar

la reiteración de iniciativas que presenta un grupo parlamentario todo lo contrario me gustaría alabar la capacidad que tienen ustedes de defender en lo que creen hasta la saciedad y de mantener un posicionamiento constante su tenacidad pero igual que entendemos su postura y la respetamos nos gustaría que comenzaran a asimilar que el resto de los grupos parlamentarios que tenemos representación en esta cámara

y constante en favor del tren de alta velocidad y aunque no les guste

somos la mayoría en esta cámara han sido muchos los debates que hemos tenido donde hemos intentado dejar claro el posicionamiento favorable del partido socialista

reiterativo pero tengo que confesarles que a los socialistas nos ha parecido interesante y oportuna esta comparecencia siempre y cuando la pudiéramos aprovechar

que mantuvo con el señor rajoy en esa reunión secreta como decían los medios de comunicación

pero vemos que al señor urkullu se le están empezando a pegar las malas costumbres o los malos hábitos del señor presidente del gobierno todavía está en nuestra memoria aquella rueda de prensa que dio el presidente en el cual se parapetó detrás de una pantalla de televisión para no dar respuesta a los ciudadanos

me pregunto dónde ha quedado el recuerdo de la pasada legislatura donde el partido nacionalista vasco pedía día sí día no que el lehendakari lópez viniera a esta cámara a comparecer

y les digo que personalmente no tengo ningún problema en que sea la señora oregui la que venga a comparecer hoy aquí porque el grupo socialista el pasado dieciséis de diciembre ya solicitamos

para que nos informara de primera mano de la reunión que mantuvo el día doce de diciembre de dos mil trece

y sobre los compromisos que adquirieron en ella el gobierno de españa y el gobierno vasco

y de la mantenida el dieciséis de enero y el resto de las comisiones convocadas además esperamos que con la comparecencia de hoy quedarnos satisfechos y de esa forma poder solicitar la retirada de su comparecencia en comisión convocada para el próximo miércoles y sin más rodeos señora consejera me gustaría comenzar a hacer una serie de preguntas y espero que me pueda contestar y no me diga lo mismo que al señor matute que le pregunte al gobierno de españa

la comunidad autónoma del país vasco y adif para la construcción de la nueva red ferroviaria para el país vasco suscrito el veinticuatro de abril de dos mil seis y actualmente en vigor

con el objetivo de que todas las obras de plataforma de toda la red del país vasco estén concluidos antes de finales del año dos mil dieciséis

qué acuerdo ha alcanzado con el gobierno central se va a proceder a la ampliación de la encomienda en caso afirmativo

todos los tramos pendientes de licitar o simplemente algunos concretos

y cuales se reserva el estado su licitación cuándo considera el ministerio de interior estarán finalizadas las obras de la y vasca de su competencia

en caso que el gobierno central haya desestimado la ampliación de la encomienda de gestión cuáles son los motivos que ha esgrimido por el ministerio de fomento para no aceptarlo

finalmente la licitación va a ser asumida por el gobierno vasco vía cupo

qué opina el ministerio sobre esta operación y en concreto va a dar el ministerio de hacienda

en el mismo pleno del mes de diciembre se acordó instar al ministerio de fomento a la presentación en dos meses de un plan detallado de inversiones con fechas de licitación y de finalización para las obras pendientes de plataforma y super estructura correspondientes a los tramos de la línea ave entre vitoria y burgos así como entre pamplona y la red y vasca todo ello ante el riesgo

se quede aislada sin conexión con madrid por la meseta castellana como parte fundamental del eje atlántico europeo hasta la frontera francesa y sin conexión con el eje mediterráneo

en caso afirmativo cuál ha sido la respuesta del gobierno del estado va a cumplir el mandato parlamentario de esta cámara vasca cuándo estima el gobierno central que podría tener elaborado dicho plan

el señor manuel niño secretario general de infraestructura del ministerio de fomento a una pregunta del diputado socialista vasco odón elorza en el congreso respondió que el gobierno central

para los socialistas esto es inadmisible señora consejera por eso le queremos preguntar han negociado con el ministerio

cuál es la reclamación que está haciendo el gobierno vasco y a que acuerdos iniciales está llegando

cuándo prevé el ministerio que estarán hechas dichas conexiones como hemos hablado en otras ocasiones en otros debates parlamentarios en dos mil doce

un cuarenta por ciento sobre lo consignado dejando la asignación en ciento noventa millónes para las obras de su competencia pero por si fuera poco el recorte realizado por el ministerio en dicho año a finales de dos mil trece nos encontramos

es decir el cuarenta y siete por ciento de lo previsto por eso señora consejera ha pedido usted explicaciones

cuáles son los motivos que ha esgrimido el ministerio le ha preguntado por qué motivo está invirtiendo porcentualmente más en otras líneas de alta velocidad como por ejemplo la gallega en vez de la y vasca cuando es esta la y vasca la que se encuentra en un corredor prioritario para europa

el gobierno vasco con el gobierno central o el ministerio las preocupaciones que tiene la comisión europea

qué opina el ministerio de estas preocupaciones en resumen señora consejera nos gustaría saber en qué punto se encuentran las negociaciones con el ministerio

vasca y nos gustaría saber si se ha planteado en dichas reuniones continuar las reuniones mensuales que mantenía adif y ets en la pasada legislatura

como he dicho en intervenciones anteriores los socialistas vascos estamos dispuestos a apoyar al gobierno vasca para que reclame al gobierno central la ampliación de la encomienda de gestión dos mil seis

pasen a ser gestionados por el gobierno vasco vía cupo pero siempre y cuando el gobierno vasco se comprometa a ejecutar en tiempo y forma

sino también los nuevos tramos que van a empezar a asumir por eso señora oregi defienda sin miedo

que respalda sin duda lo que será la infraestructura más importante de la historia de nuestro país

decir en primer lugar respecto a las referencias que han realizado algunos otros grupos sobre

la intervención del lehendakari urkullu en esta cámara ante las solicitudes de la intervención realizadas por diferentes grupos

recordar tirar de hemerotecas o sacar los datos para comprobar que las intervenciones del actual lehendakari

tanto en números absolutos como en términos relativos respecto a las respuestas que ha dado sus solicitudes de comparecencia centrándonos en lo que nos trae aquí hoy se ha solicitado por los proponentes

a fin de que ofrezca explicaciones sobre las medidas que piensa adoptar para detener lo que denomina despilfarro económico en el proyecto del tren de alta velocidad

hacerlo de modo incontrolado nuestro grupo entiende que la construcción de esta infraestructura es necesaria

sino que creemos debiera haberse ejecutado hace ya muchos años además

no se nos ocurrió a nosotros sino que forma parte de la red transeuropea de transportes número tres como bien ha explicado

decir que se trata de un gasto absolutamente controlado a falta de una

la propia administración vasca y la derivada de la encomienda de gestión por tanto despilfarro nada

nos dicen los proponentes que los fondos públicos se deben gestionar de manera adecuada y racional algo con lo que estamos totalmente de acuerdo

paralizar el proyecto y que los fondos se destinen a otros fines señora consejera no va a dedicarle mucho tiempo a debatir esta cuestión porque la verdad produce una cierta fatiga mental debatir seis veces en esta cámara sobre el mismo asunto en un periodo de un año escaso

su rentabilidad económica social y medioambiental ya fueron abordados con motivo de una proposición no de ley presentada por el grupo bildu y debatida en esta cámara el veintiuno de marzo pasado también lo fue por motivo de una moción consecuencia de interpelación de usted mismo señor matute que debatida el día dieciséis de mayo

lo debatimos con el objetivo de una pnl en este caso a propuesta del grupo socialista sobre el criterio de jerarquización

igualmente en los debates habidos sobre los presupuestos anuales de la actual legislatura se ha discutido este asunto en todas ellas de una u otra manera

y en ninguna de ellas los proponentes fueron capaces de proponer argumentos para convencer a ninguno de los restantes grupos sin embargo vuelven a la carga con el asunto argumentando ahora que el gobierno de españa no piensa construir la conexión vitoria burgos

el tramo hendaia burdeos y sin embargo ninguna de esas afirmaciones se ajustan a la realidad

y tampoco es cierto que el gobierno francés haya pospuesto sine die el tramo entre hendaia y burdeos

realizan los proponentes bildu le critica a usted señora consejera la labor de acometer las obras del tav a su paso por gipuzkoa y financiadas a través del pago del cupo dicen que no hay dinero para el tav y no hay para otras políticas sociales nuestro grupo le dice a usted que la respuesta

nos parece pertinente recordar que se trata de una actuación amparada en una encomienda de gestión y conviene

que es aquella mediante la cual una administración encarga a otra la realización de actividades que son de su competencia es una técnica

federales es decir una obra por cuenta de otro de modo que la operación en términos financieros resulte neutra en este caso como se ha dicho la obra compete al estado pero tiene también una virtualidad política

a esta obra que consideramos necesaria hacerlo desde aquí y además nos otorga la posibilidad de intervenir en la planificación y en la construcción de las mismas y no es cierto que se traigan recursos de la administración vasca para ejecutar la obra

en el pago del cupo formalmente no obstante nuestro grupo señora consejera está preocupado respecto al cumplimiento de aquella parte de la obra que compete que corresponde al estado los proyectos y obras necesarias de este corredor llevan un cierto retraso

por eso la apoyamos en su planteamiento de ampliar la misma fórmula de colaboración a otras actuaciones de este corredor

que se encomiende la gestión del nudo mondragón bergara y que ambos gobiernos trabajen conjuntamente

por la definición de estos accesos a las entradas a bilbao donostia y gasteiz y que se encomiende como digo la gestión de estas actuaciones

vía cupo sobre la segunda cuestión que plantea el proponente la de destinar estos fondos a denominadas necesidades

es importante demostrar el esfuerzo que realiza este gobierno en materia social y la prueba más evidente son los presupuestos para este año dos mil catorce en el que de los dos mil doscientos quince millónes de euros más del setenta por ciento se destina a gasto social

euros por habitante el gasto per cápita más alto de todas las comunidades del estado en materia educativa tenemos un gasto per cápita por alumno de mil doscientos veinticuatro euros por alumno también el más elevado

de producción social muy elevados una renta de garantía de setecientos noventa y seis euros por habitante y prácticamente duplicamos

comunidad por tanto no se puede poner en duda la apuesta de este gobierno por la lucha contra la exclusión social lo que podríamos llamar el modelo vasco de producción social señor matute pero para mantener estos estándares de producción social se necesitan recursos económicos se necesita que la economía

y en este sentido la mejora en infraestructuras es una inyección directa sobre el

nadie discute el impacto positivo de las inversiones logísticas sobre el crecimiento y el empleo

entendemos el compromiso con las personas y un modelo de desarrollo sostenible

de una posición competitiva en euskadi dentro del contexto internacional

por lo que desde nuestro grupo no cejaremos en el empeño de dotarnos de estas infraestructuras

por todo esto estamos de acuerdo con usted señora consejera le felicitamos por las gestiones realizadas y le animamos a seguir trabajando en esta línea

va a contar con el apoyo y colaboración de nuestro grupo parlamentario eskerrik asko besterik ez momentuz eskerrik asko aldaiturriaga jauna

el apoyo incondicional de la mayor parte de esta cámara

desde el gobierno intentaré por orden

contestándoles a todos ustedes no se preocupe porque yo me enfade no me enfado

recordarle todas las veces que le hemos enviado de muy buena fe también en este caso la información que nos han solicitado su grupo como los otros con toda la información que tenemos encima de la mesa para que recurra esa información cuando nos hace otras preguntas y no

de entrevistas radiofónicas y periodísticas

y muchas veces también descontextualizadas tiene toda la información

por tanto recurra a eso no recurra a los entrecomillados de los periódicos

desde que se empezó a trabajar en esta infraestructura y es cierto ha cambiado yo diría que ha cambiado además en muchas cosas

cuestiones de infraestructuras de movilidad ha cambiado y sigue evolucionando hacia unas necesidades mayores de movilidad de conectividad y de accesibilidad entre los diferentes núcleos urbanos entre los diferentes espacios territoriales y también para los movimientos de mercancía

creo que aceptando esa realidad cambiante creo que sigue siendo tan necesario como antes o más incluso

el señor aldaiturriaga le ha recordado también algunas cosas que me preguntaba en su segunda intervención

y también hacia europa diciéndole que algunas de sus manifestaciones en la justificación de la solicitud de comparecencia no son correctas

por alta velocidad con vitoria burgos que eso lo ha dicho oficialmente el ministerio no es así

hablado de obras transitorias o provisionales pero no ha hablado en ningún caso de dejar

y lo mismo nos ocurre también con las declaraciones o con las informaciones que tenemos de lo que ocurre en la parte francesa ahora sí estamos aislados no somos una isla no seremos una isla ahora sí estamos aislados estamos aislados

porque no tenemos los anchos internacionales eso lo vamos a resolver entre otras cosas eso vamos a resolver con esta

no estoy en un viaje a ítaca para mí en este caso el viaje no es el objetivo la infraestructura no es el objetivo el objetivo

el servicio que con esa infraestructura vamos a poder dar a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro entorno

con nosotros cercanos y más lejanos nuestro objetivo es ese el dar servicio y el hacer un cambio de paradigma en la movilidad en este país

esa es la cuestión y ver cómo interconectamos la y con las redes de cercanías y no dejar

la semana pasada continuar con las inversiones necesarias para que la red de cercanías sea cada vez más interesante y dé un mejor servicio

cuando la y entre en funcionamiento trabajen de manera combinada todas las infraestructuras también los autobuses estamos trabajando

estamos hablando continuamente de la intermodalidad de la multimodalidad en eso estamos no estamos en ítaca estamos trabajando y no estamos en dios proveerá estamos en a dios rogando y con el mazo dando me pregunta usted por la rentabilidad económica social y ambiental

de los otros parlamentarios también que lo hemos hablado muchas veces

lo hemos trabajado lo hemos discutido están ahí los documentos

por el que usted me pidió cuentas y que le ha recordado también algún otro compañero parlamentario

unos estudios de evaluaciones económicas sociales no se lo voy a repetir está ahí

social y ambiental no es una rémora

esta infraestructura al revés es una gran oportunidad es una gran oportunidad y debemos ser capaces de aprovecharla y dejarnos de discutir cosas que ya no tiene sentido lo que tiene sentido es que discutamos de cómo poner en servicio un

un servicio que sea competitivo y que sea atractivo para toda la sociedad vasca señor maneiro de upyd

porque la verdad es que ha hecho un repaso en algunos de los puntos

de lo que pueda ser la buena gobernanza

del gobierno al que pertenezco o sea que le agradezco estamos trabajando con mucho empeño

muy escrupulosos en las priorizaciones de obras de esta y de otras de la utilización del dinero público evidentemente estamos trabajando

primero las necesidades que se han establecido como prioritarias en el marco del gobierno y estas son como ustedes bien saben empezando por las necesidades sociales por eso como ustedes bien saben también de diferentes comparecencias en la comisión

departamentales nuestros presupuestos han podido ver

tiene mi departamento y por tanto creo que ese ejercicio de priorización estamos obligados lo estamos haciendo y lo estamos asumiendo de una manera responsable

pero desde luego responsable también hacía referencia a que se hacen en algunos casos se hacen obras a costa de trazados de media distancia cercanías que son importantes comparto totalmente hay que hacer hay que seguir hay que seguir con la inversión

y tenemos que conseguir como estamos consiguiendo en algunos puntos la mejora del servicio

detectar muy bien cuáles son los puntos en los que una inversión supone una mejora del servicio y acometer esos puntos sea el caso de las obras que estamos haciendo por ejemplo en el entorno de eibar en amaña ardanza

que repercutirán en una mejora del servicio importantísima en esa zona conocida como el tranvía del deba para ellos

sido capaces de poner ya trenes directos a bilbao de forma

un servicio cómodo y fácil para los viajeros competitivo con el transporte por carretera porque creo que todos coincidimos en esta cámara aunque me han entrado dudas del señor matute que el tren es el medio más sostenible de transporte que conocemos a la señora iturmendi también agradecerle

creo que ha aportado una serie de datos que son interesantes y que comparto efectivamente estamos

con el convenio de seguimiento estamos trabajando en los convenios

con las comisiones de acceso a las ciudades las comisiones de desarrollo de seguimiento de lo que son los trabajos hay comisiones más técnicas comisiones más políticas todas ellas están funcionando algunas de ellas como bien usted ha recordado

por tanto creo que eso es una buena noticia y son resultados de las gestiones y de los trabajos que hemos venido realizando desde el minuto uno español de manera discreta que no secreta trabajamos con el gobierno español pero no

encuentros ni todas las llamadas de teléfono ni todos los correos electrónicos aparecen en los medios de comunicación señor zaballos

nos reunimos negociamos y efectivamente estamos en el marco del convenio de encomienda y usted me ha hecho un montón de preguntas a pesar de que está de acuerdo con la y cosa que le agradezco ese apoyo no tenía duda pero me ha hecho usted un montón de preguntas también

bien me pregunta si he tratado con el gobierno español sobre la ampliación del cupo sí también cuándo estarán terminadas las obras

el riesgo de aislamiento si vamos a hacer un plan bien todo esto está en el marco esas reuniones con el gobierno español y efectivamente nosotros le hemos propuesto al gobierno español como ya saben ustedes también porque lo hemos hablado muchas veces

el poder hacer una ampliación de la encomienda y nosotros hacer las licitaciones

del nudo que es lo que falta de licitar y el tramo de atxondo abadiño que es el otro

se convierte en ese nudo gordiano que hay que desatascar porque los plazos que tiene de construcción son largos y por tanto si no se licita ya

con unas fechas de terminación mucho más distantes de las que nos gustaría qué plazos

no nos dice no nos dice y se lo pregunto

pero no nos dice cuando el gobierno español ponga la fecha de licitación

ese mismo día yo le diré la fecha de finalización mientras no tengamos la fecha de inicio

no podemos poner la fecha de finalización es imposible como decía

es el problema que en este momento tenemos entre manos esa falta de licitación del nudo de bergara

hay otros tramos u otras zonas

que siguen avanzando con presupuestos del gobierno español es cierto que el gobierno español está poniendo

y lo que nos contestan cuando preguntamos en este sentido

y que le preguntemos al señor montoro pero el ministerio de fomento tiene un dinero

de infraestructura de alta velocidad que en su mano está priorizar y yo no quiero hacer agravios comparativos

tiene en su mano el ver los presupuestos generales del estado y ver cuál es el ejercicio de priorización que se hace dentro del ministerio de fomento y a qué zonas se dedican dineros

en estos momentos de penurias económicas para todos

en cuanto a riesgo de aislamiento le digo lo mismo que le he dicho al señor matute aislados ahora

obra o parte de la obra nos van sacando

a una red perfectamente vertebrada y vertebradora también me hablaba de un plan del plan de bueno nosotros es otra de las cuestiones que le pedimos al gobierno español insistentemente

entre dos administraciones y se está trabajando con lealtad institucional debe de haber una planificación compartida aunque cada uno haga su parte nosotros desde luego en lo que nos toca en cada reunión tienen un dossier de desarrollo

perfectamente cuantificado y cualificado perfectamente dónde estamos qué pasa si hay una incidencia si no la hay

todo lo mismo estamos pidiendo no lo hemos conseguido

señor zaballos claro que les pido explicaciones y sabe cuál es la contestación que tengo razón que tenemos razón que este gobierno tiene razón que estamos trabajando de manera leal que estamos trabajando bien

que en nuestra reclamaciones deque el nudo debe de ser licitado inmediatamente comparten

prioritaria dentro de las prioritarias porque es la que nos conecta porque es una red transeuropea y el paso a europa somos nosotros hay que ver también nos dan la razón pero montoro no nos da dinero ahí estamos

las reuniones mensuales o que no pierda las reuniones mensuales que se hacían siempre bueno esas reuniones se continúan se han continuado y se continuaran las reuniones entre adif y ets nunca se han parado las reuniones entre adif y ets

continúan y continuaran funcionan muy bien y es donde nosotros

etcétera y me dice que defienda sin miedo la y para terminar me ha dicho eso no se preocupe soy inasequible al desaliento yo también como decía la señora iturmendi un día sí otro también

a veces de manera más pública y a veces de manera más discreta utilizando todas las vías y todos lo medios

porque creo que esta infraestructura es necesaria para este país es necesaria para todos nosotros y es necesaria para todos nuestros ciudadanos

más que darle las gracias y efectivamente comparto plenamente que no podemos dejar de recordar

ante el gobierno del estado señor matute no es

es porque es así es porque es así y porque yo no soy una representante del gobierno español lo sé pero las preguntas que yo le puedo contestar son las que puedo contestarle y cuando hay cosas que son competencia de otra administración hay cosas que hay que preguntar donde hay que preguntar

se me ha quedado una cosa que creo que todos ustedes de alguna manera

sobre la ampliación de la encomienda como he dicho antes nosotros creemos que lo fundamental es licitar ese nudo le hemos propuesto al gobierno español todas las fórmulas por nuestra parte

si ellos licitan si mañana llega un aviso del ministerio de fomento que han puesto en el boletín oficial el nudo los cinco tramos del nudo y el otro tramo que falta

también estamos dispuestos le hemos planteado diferentes escenarios los tienen
y estamos esperando a la contestación cosa que no hemos recibido todavía eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea

eskerrik asko presidente andrea yo le voy a empezar reconociendo una cuestión

en la misma realidad queda de manifiesto que el apoyo en esta cámara es decir el de la mayoría de los grupos parlamentarios a excepción de eh bildu es claro a favor de la y vasca eso ya lo sabíamos antes de venir a este debate de hecho no era el objetivo por eso yo no he querido

diecinueve preguntas y no me han contestado a ninguna lo siento

con cuánto dinero va a costar mantener la infraestructura y la superestructura es decir todo el trazado con cuánto dinero tenemos que disponer todavía hoy o vamos a tener que disponer de nuevo para esa encomienda de gestión vizcaína con cuánto dinero nos está retornando de ese dinero que parece que no pagamos nadie pero ustedes dicen que no lo pagamos nosotros el partido popular según lo que dicen ustedes tampoco lo está pagando luego no sabemos quién lo está pagando igual tenemos un mecenas extranjero que nos está financiando el proyecto

es vital para sacarnos de este aislamiento brutal en el que vivimos lo único evidente es que usted no ha contestado a las preguntas que eran preguntas que lo único que intentaban parte de la ciudadanía que como he señalado no es de un estudio de bildu que es del gabinete de prospecciones sociológicas del gobierno vasco referido a un estudio respecto al dos mil doce y nada parece indicar que eso ya se haya subsanado adolece de falta de información desconoce los motivos

que se pretenden realizar no me ha respondido sobre las estimaciones del transporte de mercancías es eso lo que determina la rentabilidad económica porque en función del número de pasajeros y en función del número de mercancías uno sabrá si la infraestructura es más o menos viable y usted no me ha respondido no me ha respondido por ejemplo

se pretendían como rentables desplazamientos de más de seis millónes de pasajeros y de ocho en algunos casos no se está llegando ni a cuatro y cinco millónes por tanto no se está consiguiendo y sin embargo para un tramo como este se necesitan

que es posible que haya seis millónes de desplazamientos anuales en el tav para ir de donosti a madrid o de bilbao a madrid cuando no lo consiguen en el de barcelona madrid

no me ha querido contestar al coste del mantenimiento porque probablemente decir a los ciudadanos y ciudadanas que además de todos los miles de millónes que va a costar el tav también va a haber que seguir manteniéndolo con una inversión de más de quince millónes anuales pues resulta doloroso y resulta que probablemente así

y se nos dice que estamos aislados pero aislados de qué cómo se va a madrid a negociar con el ministerio por teletransporte

pues para que usted sepa yo estoy a favor de una red por un tren social yo estoy a favor de un tren social y estoy a favor de la velocidad alta que no de la alta velocidad y usted y yo sabemos que no es lo mismo y probablemente más gente y usted sabrá

y dé más sentido al viaje que al objetivo y que en el viaje estén enriqueciéndose de manera brutal aquellos que luego

más que proveer o pegar con el mazo como decía usted ahora lo que tendrían que hacer es una estimación más adecuada más real y más exacta de lo que supone cada inversión en infraestructuras que realizan

y la explicación que usted ha dado la explicación sobre el carácter nuclear y vertebral de esta infraestructura

podía dar en su día para defender el aeropuerto de castellón espero que la conclusión no sea la misma que tengamos igual que ellos tienen un aeropuerto sin aviones

tengamos un trazado ferroviario sin trenes capaces de transitar por ello porque no hay personas que tengan dinero para pagar esos trayectos y porque no hay empresas que tengan mercancías que transportar

que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades sino que determinadas acciones de gobierno nos están haciendo vivir por encima de nuestras necesidades

del cambio de paradigma en la movilidad ustedes quieren provocar un cambio de paradigma pues atiendan a que el noventa y ocho por ciento de los desplazamientos en este país en esta comunidad

porque no estamos aislados y lo ha señalado muy bien y finalizo la representante del partido popular usted lo ha dicho muy bien esto nos une a los gobiernos de españa y al gobierno vasco y nos vertebra nos vertebra como país como españa y esa es la realidad porque cuando hablan del dinero y cuando hablan del precio yo solamente les voy a dejar una interrogante porque es cierto que vamos a poder hablar nuevamente de esto que tanto apasiona la semana que viene cómo es posible

entre dos gobiernos que pueden tener una legítima aspiración de país diferente el gobierno vasco puede querer hacer de este país un país soberano los representantes del partido popular evidentemente no y todos están disponiendo

no de no estar aislados sino de estar indisolublemente unidos a una realidad que a lo mejor esta sociedad quiere cambiar y además le podría costar menos y con proyectos menos lesivos para el medioambiente besterik ez

al menos antes a los representantes del partido popular y del partido socialista y en concreto a la señora iturmendi cuando reivindicaba la modernidad

es que lo que se ha hecho en el conjunto de españa en los últimos tiempos en relación a esta cuestión no es ni modernidad ni progreso se ha acercado en muchas ocasiones muchos más a lo que podría denominarse como cacicada

upyd se sitúa en la equidistancia según la representante del partido popular es decir como hubiera determinadas posiciones que son puras y naturales y el resto de partidos políticos tuviéramos que elegir entre una u otra nosotros defendemos lo que defendemos y lo hemos explicado y esto no es equidistancia

y más modernidad que lo que efectivamente han hecho los distintos gobiernos de españa

evidentemente eh bildu no es el progreso evidentemente y el progreso tampoco es el derroche de dinero público y el progreso tampoco es las cacicadas ni la falta de información ni priorizar determinados tramos en lugar de otros que son claramente más necesarios por simples

intereses espurios ni el provincianismo ni la falta de rigor

el progreso señores del partido popular y del partido socialista es el rigor

de los recursos públicos es llevar a cabo determinadas inversiones

a estudios vinculantes de rentabilidad de necesidad real de demanda social y de conveniencia económica justo lo que no se ha hecho en españa durante largas décadas a esta cuestión y en relación a muchas otras obras el progreso es reconocer errores la buena gobernanza atender al interés general

o la cultura de la eficiencia eso es en nuestra opinión el progreso y lo que reivindicamos ciertamente me hace gracia que cuando se debate esta cuestión los representantes del partido popular y del partido socialista digamos que vienen a confrontar para intentar demostrar digamos quién ha invertido y ejecutado más en relación a esta cuestión

y compararse para saber quién de ustedes ha timado más a la sociedad en relación a esta cuestión

quién ha sido menos serio quién ha sido menos riguroso eso también sería interesante en lugar de plantear una carrera haber quién es el que ha aportado más a esta cuestión

los ciudadanos evidentemente quieren saberlo por lo tanto y en conclusión el tav el tren de alta velocidad en euskadi debe hacerse y debe hacerse sin prisa pero sin pausa o sin pausa

estos tramos efectivamente son prioritarios respecto a otros tramos por ejemplo los tramos de galicia así lo hemos dicho no sé exactamente qué es lo que ha dicho el partido socialista

más prioritarios que otros y estos efectivamente lo son pero en todo caso lo prioritario son las políticas sociales el estado de bienestar y la salida de la crisis esto es lo prioritario

y en fin esto es lo que yo le pido a la consejera del gobierno vasco que tenga en cuenta qué es realmente lo prioritario y no se deje arrastrar en fin ni por catastrofistas ni por demagogos nada más y gracias

gracias presidenta por empezar por el señor maneiro que me ha precedido

precisarle que sí es interesante saber

testar ese rigor pero yo le digo que cuando llega el partido popular al gobierno de españa la deuda de adif era

esa era la deuda y nosotros somos tan rigurosos que solamente licitamos lo que vamos a pagar y ha habido que pagar facturas

esa es la rigurosidad con la que trabaja el partido popular

que no sean equitativas en esta cuestión estamos aquí y a veces nos olvidamos de que el resto de españa es muy distinto o muy diverso

está trabajando en esta cuestión con equidad y lo digo porque es verdad que nos gustaría que entrase más dinero

es verdad que fuese todo más acelerado siempre pagando porque es nuestro estilo pagar

que lo primero es que tiene que haber equidad en las infraestructuras señorías hay ciudades como salamanca

que no ha tenido nunca para que hablen ustedes de nichos devotos y

para que las mercancías puedan salir por el corredor atlántico y puedan llegar al país vasco a través de esa línea electrificada que no han tenido nunca y como esta capital

que se está tratando de actuar con equidad

más allá de los discursos y la amenaza del señor matute que volverá creo que ha sido así volverá aquí estaremos señor matute no se preocupe

también nosotros lo primero decirles que nos congratulamos

de esta cámara esté a favor nos congratulamos de que la comisión de seguimiento

las condiciones de seguimiento porque son varias funcionen nos congratulamos

avanza con determinación eso sí como les decía licitando solo lo que puede pagar y yo creo que el tramo abadiño atxondo que es verdad que es crucial

su licitación y también congratularnos porque todo será de alta velocidad

empezó con este proyecto y será un gobierno del partido popular
el que lo finalice muchas gracias eskerrik asko iturmendi

muchas gracias señora presidenta señor maneiro en el debate que tuvimos en el mes de diciembre usted posteriormente me llamó la atención porque no le había contestado entonces no quiero

no ha sido la gestión que ha realizado el partido socialista en el gobierno de madrid ni tampoco la del partido popular pero me sorprende cómo no nos hemos dado cuenta que es usted el progreso encarnado sabe lo que pienso muchas veces cuando le escucho hablar que

de progreso es lo que aparece en las siglas de su partido y nada más por lo tanto no venga usted ha dar lecciones a nadie de lo que es el progreso de este país y

espero por el bien de todos los españoles que en dos mil dieciséis que es la fecha de finalización el señor rajoy no esté en la moncloa señora arregi aunque yo le pregunte mucho

y aunque le pueda llegar a incomodar le digo que comparto con usted plenamente la defensa de la y vasca comparto con usted que se amplíe la encomiendo de gestión

comparto con usted que el gobierno central no prioriza de la misma forma

usted no ha dado ningún ejemplo yo en mi intervención sí lo he dicho y lo vuelvo a repetir galicia

pero galicia no está contemplado en ningún corredor prioritario para europa

por lo tanto ahí demuestra el gobierno central que de verdad no defiende

no se lo digo porque le cuestione que no lo esté haciendo sino lo que quiero es que

hay partidos en esta cámara que le van a apoyar hoy se ha demostrado claramente que salvo eh bildu el resto de esta cámara está a favor de que esa infraestructura siga adelante pero como comprenderá como usted le ha dicho al señor matute que no se fíe de las noticias que salen en los medios de comunicación o en las radios y para no fiarnos de ello lo que

y usted lo que tendrá que hacer es responderlo muy amablemente como lo está haciendo pero desgraciadamente tengo que lamentar que a la mayoría de las preguntas que le ha realizado no me ha dado respuesta

no sé si porque se le ha pasado a responderme en su intervención

tengo tres alternativas como parlamentario son volvérselas a hacer en este turno

y la última es pasárselas por escrito para que usted con tranquilidad pueda reflexionar y contestarme sin ningún problema

se las pasaré por escrito ya que llevo un tiempo sin agobiarla con preguntas la he dejado un poquito tranquila pues empezaremos de nuevo con la tanda de preguntas

y comunicarle que vamos a proceder a retirar la solicitud de comparecencia de usted para la semana que viene en la comisión de medio ambiente y política territorial y para que vea que la voluntad

y no poner trabas al gobierno del partido nacionalista vasco del señor lehendakari

para solicitar al gobierno central la inmediata licitación del nudo de bergara y si no lo hacen ellos que permita que a través de encomienda de gestión lo haga el gobierno vasco esperamos ver cuál es el posicionamiento de esta cámara yo le adelanto señora consejera

el partido nacionalista vasco también le apoye muchas gracias eskerrik asko zaballos jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den aldaiturriaga jaunak dauka hitza

se han confundido de foro se dedican a traer a esta cámara

a la nueva red ferroviaria vasca lo que ocurre aquí cuando como todo el mundo sabe

no es cierto que nuestro proyecto tenga las mismas características que el promovido por la administración general del estado nuestro proyecto

y además plantea no es de alta velocidad sino de velocidad alta como bien sabe el proponente y ha hecho un juego de palabras para intentar

ya se ha producido en esta sociedad además respecto a los grupos que componen bildu

historia pasada sobre este asunto así por ejemplo hace escasos diez años eusko alkartasuna manifestaba la urgente necesidad de construir esta infraestructura

izquierda unida frente a la denominada

conocida como u la famosa u aralar a su vez planteaba ni la

y todo esto por no hablar de los planteamientos de hb en

y algunos municipios en concreto me estoy acordando de hondarribia en este momento planteaba exactamente la urgente necesidad de que este tren pasase por la ciudad

se producirían dos efectos inmediatos uno renunciar a la utilización de la obra pública como palanca para generar empleo y eso en los tiempos que corren

aumentarían en centenares o miles las personas de la lista de desempleo en euskadi y

con lo cual haríamos tomaríamos una mala decisión en defensa de los intereses de los ciudadanos vascos

a implicarse en la pronta construcción de esta infraestructura

estación más de nuestro largo vía crucis en la puesta de conectarnos por ferrocarril con europa señora consejera

debemos seguir peleando para conseguir su construcción en este sentido nos parece bien que usted haya realizado una serie de gestiones para conseguir que se reúnan las comisiones de seguimiento de la obra con carácter general y más específica de las entradas a las tres ciudades finalmente

que cuando salgamos de la crisis nos iba pillar en clara inferioridad respecto a otras regiones es trabajar para que esto no sea así por eso le animamos a seguir trabajando en orden a la consecución de este objetivo de construir una nueva red ferroviaria para euskadi eskerrik asko

guztioi creo que en esta chanda solo me queda prácticamente agradecerles el apoyo mayoritario

una puntualización al señor matute exclusivamente usted tiene todos los datos señor matute sí los tiene

los datos económicos los datos de explotación las previsiones las estimaciones están publicados sí en el libro gordo ese están entre otros sitios

o no se los quiere creer o algo de esto pasa

son esos y si me pregunta le voy a volver a dar los mismos porque son esos no cambio cada día y no trabajamos con improvisación trabajamos con rigor y por eso los datos son todo el rato los mismos eta orduan

el impacto económico de las obras de la y que también están en esos informes que le recuerdo señor matute

favorable y es un impacto que tiene muchos efectos tiene efectos directos indirectos efectos inducidos tiene

de los sectores en los que se realiza en los sectores que tienen que aumentar su producción para satisfacer estas nuevas demandas de obra un efecto indirecto que todos los directamente afectados

porque este aumento de producción genera un mayor empleo por tanto un incremento de las rentas de trabajo hay un incremento de la población ocupada durante el tiempo en que se realizan las obras y también

con la explotación de la red pero además de todo eso hay a futuro con la puesta en la explotación tendremos ahorro de tiempo que hará posible mejor utilización del tiempo tanto productivo como de ocio menor siniestralidad

es el más seguro de los medios de transporte y también la sostenibilidad medio ambiental debido a la menor emisión de gases de efecto invernadero a su mayor eficiencia energética pero todo esto ya lo sabe usted

muchas veces por tanto laburbilduz nire aldetik nik uste dut